josé antonio suso pérez de arenaza jone

luis javier tellería orriols estíbaliz larrauri aranguren

maitane ipiñazar miranda unai grajales

gurrutxaga uranga eva juez

díez antxustegi gorka álvarez martínez

berrojalbiz zabala aitor urrutia oianguren

lore martinez axpe unai fernandez de betoño

carlos iturgaiz angulo carmelo barrio baroja

jon hernández hidalgo david

atutxa sainz jon andoni barrio baroja carmelo

blanco de angulo eba casanova alonso iker

gorrotxategi azurmendi miren grajales rodríguez unai

tellería orriols luis javier ubera aranzeta rebeka

a don iñaki aguirre arizmendi y a don txarli prieto san vicente como miembros de esta cámara que me siguen en edad

los dos primeros miembros más jóvenes presentes para que pasen a integrar como vicepresidentes y secretarios respectivamente la mesa de edad

como presidente hoy de la mesa de edad en la constitución de esta décimosegunda legislatura del parlamento vasco

permítanme que incumpla esta indicación aunque les prometo que no les

permítanme que mis dos hijas y mi hijo su ama bego

puedan encontrar en el diario de sesiones la huella de su aita como presidente por un día del órgano donde la soberanía del pueblo vasco no es la primera vez que formo parte de una mesa de edad ya que con veintiséis años formé parte de la mesa de edad que me eligió

por allí era el más joven de la mesa ahora lo soy por ser el que más experiencia tiene iniciamos esta legislatura

de los tres territorios históricos por ello

por un día que hace cuatro décadas desempeñó

lehendakari zaharra fue su presencia como electo tras

ya otorgaba legitimidad histórica a aquella naciente cámara

nuestro parlamento está consolidado es la expresión de la democracia y de la diversidad política reflejo de la voluntad de la ciudadanía

antecedieron nos ponen el listón muy alto y nos obliga

en beneficio del bien común hemos sabido superar la crisis económica y la violencia terrorista que asolaban este país en mil novecientos ochenta

va a ser muy complicada tanto para los grupos que apoyan al futuro gobierno como para la oposición desde mi responsabilidad por un día

que seamos capaces de llegar a un mínimo común denominador para hacer frente

económica y social que está produciendo esta pandemia global desde mi responsabilidad por un día le pido a la sociedad vasca

el agravamiento de esta pandemia mascarilla distancia social

y mi atrevimiento al dejar este mensaje a sus señorías pero antes de comenzar con la elección de la nueva mesa les pido que dediquemos un minuto de silencio reflexión y recuerdo dirigido hacia todas las víctimas que ha dejado el coronavirus

y terminemos con un aplauso de reconocimiento

hacia todas las personas que han dado lo mejor de sí mismas y siguen haciéndolo para luchar contra esta enfermedad eskerrik asko guztioi

se suspende la sesión durante quince minutos para que los miembros de la cámara

para los distintos cargos que integran la mesa de la cámara recomendamos

en la medida de lo posible para evitar corrillos y aglomeraciones y mantener las medidas de seguridad necesarias se suspende la sesión